cuya aprobación corresponde a esta cámara y ello en un trámite que no puede considerarse menor ya que de la aprobación de estas cuentas depende también que el progreso social de euskadi prosiga un año más en términos fecundos como ya señalé en mi comparecencia ante la comisión

el pasado día seis de noviembre se trata de un proyecto presupuestario que se ha elaborado en una coyuntura en la que la economía vasca describe un perfil de progresiva recuperación

está sujeta a riesgos a la baja más que por factores endógenos por la multitud de elementos de incertidumbre que pesan sobre la evolución de nuestro entorno

su compromiso con el reforzamiento del sistema vasco de protección social conformado por los servicios y prestaciones públicas esenciales en especial en el ámbito de la salud de la educación y de las políticas de cohesión social y reitera su apuesta por acompañar la expectativa de crecimiento

situaré el proyecto de ley de presupuestos generales para el próximo ejercicio en su contexto económico

de dónde venimos en qué situación económica nos encontramos y cuáles son los parámetros de estabilidad pactados con el estado en el pasado mes de julio para confeccionar los presupuestos de este año y los venideros la segunda reflexión será para describir las características más reseñables del gasto e ingreso público del ejercicio dos mil dieciocho

y para terminar comentaré también de manera telegráfica el resultado de las negociaciones con los grupos políticos para poder sacar adelante este proyecto

marcado por un cierto optimismo bi mila hemezortziko

semestre del año diecisiete el conjunto de la economía mundial creció del orden del tres coma cinco por ciento

que el fondo monetario internacional ha situado en el tres coma seis por ciento se cumplirán con una alta probabilidad el buen tono de la economía mundial se mantendrá el próximo año

un crecimiento del tres coma siete por ciento estados unidos está dejando atrás las dificultades puntuales que padeció en el año dos mil dieciséis y va recuperando el tono expansivo

del dos coma uno por ciento y cuatro trimestres continuos de aceleración las previsiones no dan mucho margen de mejora

para el presente año y para el próximo juega a su favor el fuerte impulso

en el cuatro coma tres por ciento que favorecerán el crecimiento del consumo

la unión europea tiene una evolución similar que alcanza un ritmo de crecimiento del dos coma dos por ciento en el primer semestre del dos mil diecisiete

del dos coma tres por ciento y que se situará en el dos coma uno para el próximo ejercicio todas las economías grandes del área se han sumado a esta aceleración

en tasas si bien todavía destaca el impulso de la economía española

alemania a un dos por ciento pero con francia ya creciendo al uno coma siete e

se resiente por la incertidumbre generada por el brexit y anota

en la primera mitad del año el pasado mes de octubre la confianza económica en europa se sitúa en niveles no conocidos desde el año dos mil siete e incluso la española alcanza su mayor valor desde el año dos mil quince para el conjunto de los países emergentes

muestra un perfil de suave aceleración para este año y el próximo con un resultado del cuatro coma seis para el año dos mil diecisiete y del cuatro coma nueve dos mil dieciocho los países asiáticos con china

volverán a ser los motores del área pero la mejora esperada proviene de rusia latinoamérica y de áfrica que conseguirán crecimientos

gracias a la recuperación del precio de las materias primas

del orden del dos coma ocho por ciento la inercia que le proporcionan una baja inflación una política monetaria expansiva

la fuerte generación de empleo y la recuperación del entorno es mayor de la prevista la creación de empleo es uno de los pilares de esta fase expansiva del

el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentó un dos coma uno por ciento lo cual implica que se han recuperado ya unos cuarenta y cinco mil empleos desde el año dos mil catorce aunque faltan

al nivel existente antes de la crisis con toda esta información

ha revisado el cuadro macroeconómico para el periodo dos mil diecisiete dos mil dieciocho y el gobierno vasco anticipa un crecimiento

del dos coma nueve por ciento para dos mil diecisiete y del dos coma cuatro para el año que viene la creación de empleo se fija en un uno coma siete por ciento cifra que sugiere que se crearán otros quince mil quinientos puestos de trabajo a tiempo completo y que la cifra media del próximo año superará los novecientos treinta mil empleos cada vez más cerca

dos mil ocho la tasa de paro seguirá descendiendo y se acercará ya en dos mil dieciocho

del diez por ciento el escenario macroeconómico descrito contextualiza un proyecto de presupuestos que además debe de tener en cuenta el marco plurianual con sus tendencias económicas y con una senda de corrección de los desequilibrios para completar el escenario externo de las cuentas del dos mil dieciocho que ahora presento

perder de vista que el proceso de consolidación fiscal que afecta a las políticas económicas y presupuestarias de la unión europea y por tanto también a las de euskadi limita enormemente la capacidad de agregar ingresos vía déficit y deuda estos parámetros para el siguiente trienio son como refleja la memoria económica del presupuesto

de la comisión mixta de concierto económico de julio de este año todo ello supone que la política presupuestaria debe hacer un esfuerzo de adecuación a la situación coyuntural que como decía apunta hacía una reducción del crecimiento económico de manera que compense en alguna medida los efectos de la misma en segundo lugar ciñéndonos a las cifras de los presupuestos para el ejercicio dos mil dieciocho

principales características antes de nada debe decirse que se trata del primer presupuesto a aprobar

con el estado en relación a las liquidaciones de cupo de los ejercicios anteriores y a la metodología de determinación del cupo del país vasco para el quinquenio dos mil diecisiete dos mil veintiuno por tanto se trata del primer presupuesto a aprobar tras alcanzar

para el resto de la legislatura y algún ejercicio más estatuarekin legegintzaldia bukatu arteko eta beste

onartutako lehen aurrekontua da si bien resulta una envolvente muy coyuntural este presupuesto sin duda es deudor

con consecuencias económicas muy positivas en términos de actualización económica de los acuerdos sobre el cupo descritos ello ha permitido

de los últimos meses en este mismo foro parlamentario afrontar y adelantar algunos gastos que naturalmente hubieran debido realizarse en el año dos mil dieciocho

que viene en lo que hace al gasto con cierta tranquilidad prueba de ello es legal para el adelanto del cuarto de paga extra del

que estaba aún por recuperar por parte de los funcionarios de la comunidad autónoma de euskadi y cuyo abordamiento estaba en principio previsto para el próximo ejercicio como segunda característica debe señalarse desde un punto de vista más estructural y de construcción del modelo presupuestario

que este ejercicio se ha tratado de ensayar un alineamiento de las políticas públicas con la planificación estratégica del gobierno para la legislatura o al menos para con las finalidades económicas de los planes del gobierno en el ejercicio dos mil dieciocho es más que nada un ejercicio de realismo presupuestario de la actividad de planificación estratégica del gobierno que esperamos tenga una evaluación y seguimiento específicos en los ejercicios sucesivos

en términos globales los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el dos mil dieciocho van a contar con unos recursos totales

millónes de euros lo que supone un incremento del tres coma nueve por ciento

absolutos se plantean

en el marco de un escenario de consolidación fiscal con el objetivo de llegar en el año dos mil veinte

y a un nivel de deuda inferior al trece por ciento del producto interior bruto de hecho sin la amortización de la deuda y el efecto de la y se observa

de doscientos noventa coma cuatro millónes de euros esto es un crecimiento del dos coma nueve por ciento en relación al año anterior

a los ingresos las aportaciones de las diputaciones forales presentan un incremento de cuatrocientos veinte coma uno millónes de euros pasando

del ejercicio diecisiete a los nueve mil quinientos veintitrés coma tres millónes de dos mil dieciocho esto supone que el ochenta y dos coma nueve por ciento de los ingresos

de las diputaciones forales asimismo también se ha configurado en el marco de los compromisos acordados en el seno de la comisión mixta de concierto

actual hasta el cero coma cuatro del año dos mil dieciocho cerca

menos de disponibilidad y que la deuda pública no ha de ser superior al catorce coma dos por ciento del producto interior bruto en cuanto a la amortización de la deuda

de euros pasando de los setecientos ochenta y ocho coma cuatro de este año a los mil ciento trece coma nueve el próximo analizando la evolución de las inversiones

y aumento de activos financieros se observa un incremento hasta los novecientos cuarenta y dos coma seis millónes de euros lo que supone sesenta y cuatro coma seis más que en dos mil diecisiete este proyecto de presupuestos ajusta la ejecución de los créditos de la gestión de la nueva red ferroviaria vasca la y vasca y la variante sur que pasa de los trescientos cincuenta coma cinco millónes considerados en el año dos mil diecisiete

el gobierno vasco considera que esta cifra es un importe ajustado a la programación prevista las inversiones una vez rebajados los créditos de gestión de la y vasca y de la variante sur se elevan un siete coma cuatro por ciento el gobierno va recuperando el ritmo inversor en el marco de la recuperación económica en el que se encuentra la economía vasca

de ciencia tecnología e innovación dos mil veinte ya que el gobierno destinará cuatrocientos treinta y tres coma tres millónes de euros distribuidos en los departamentos de educación salud desarrollo económico e infraestructuras gobernanza pública y autogobierno

lo que supone un aumento de veintidós millónes de euros un cinco coma cuatro

con lo que se cumple y supera el compromiso adquirido por parte del ejecutivo si se analiza el proyecto de presupuestos para el año dieciocho desde la perspectiva de la clasificación económica

recoge el incremento de la retribución del personal al servicio de la administración en un uno coma cinco por ciento y además se incluyen las aportaciones a la entidad de previsión social itzarri con medio punto que podrá elevarse hasta un punto

si así lo acuerda el consejo de gobierno en el capítulo cuarto de gasto transferencias y subvenciones se presenta un volumen de tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve coma nueve millónes de euros una cifra similar tres mil quinientos diez coma ocho millónes de euros

gastos de funcionamiento que incluye la dotación del contrato programa

las actuaciones que engloban los tres capítulos de gasto anteriores

de la renta de garantía de ingresos o la financiación del sistema educativo vasco por citar algunas de las actuaciones que incorporan mayores cuantías de gasto

gastos financieros estos presentan doscientos treinta y tres coma tres millónes de euros frente a los doscientos cuarenta y ocho coma tres del año anteriores es decir quince millónes de euros menos

sigue siendo fiel a sus compromisos de garantizar y mejorar las políticas públicas y potenciar el desarrollo económico y el empleo así el setenta y siete por ciento del presupuesto se destina a gasto social salud educación y políticas sociales

políticas de inversiones públicas quiero señalar también que la garantía de unos servicios públicos de calidad pasa por la atención a las condiciones en las que desempeña su trabajo el personal

tras las inevitables dificultades derivadas de una dura crisis el gobierno se ha propuesto como objetivo el dar pasos claros en la mejora de las retribuciones

salud es el departamento que experimenta el mayor incremento

lo que supone ciento veintiocho millónes de euros más que en el año dos mil diecisiete

y las de farmacia con un importe superior a los quinientos dieciocho millónes además este año se contemplan inversiones en osakidetza por valor de sesenta y seis coma ocho millónes

lo que supone un incremento del uno coma nueve por ciento respecto a dos mil diecisiete en términos relativos

a los cincuenta y uno millónes de euros siendo este el segundo departamento que más crece en relación al año diecisiete

va a recibir un fuerte impulso adicional en el gasto a ejecutar

del acuerdo a la comisión mixta de concierto económico de modo que si se tuvieran en cuenta el crecimiento del gasto del departamento sin considerar gasto de personal sería de un tres coma cinco

el departamento de empleo y políticas sociales el tercero en cuantía presupuestaria contempla un presupuesto de mil catorce millónes de euros la renta de garantía de ingresos experimenta una actualización del uno coma cinco por ciento al igual

y junto con la prestación complementaria de vivienda supone un gasto de cuatrocientos noventa y uno coma tres millónes de euros las ayudas de emergencia social se mantienen en veintisiete millónes de euros la dotación de las políticas activas por otro lado se incrementa en quince coma seis millónes de euros dentro

hasta los trescientos treinta y tres coma cinco millónes por su parte los datos del departamento de desarrollo económico e infraestructura requieren de una explicación

de los créditos de gestión de la nueva red ferroviaria vasca en dos mil diecisiete el departamento gestionó un presupuesto de seiscientos noventa y cuatro millónes de euros

presupuestados para estos fines el dos mil dieciocho el departamento cuenta con setecientos veintisiete millónes de euros tras hacer la misma operación con la nueva cantidad presupuestada es decir ajustando

y de esta manera experimenta un crecimiento del cuatro coma ocho por ciento que implica un incremento absoluto de treinta y tres coma tres millónes de euros

en catorce coma tres millónes de euros y los programas de industria agricultura y pesca que han aumentado

millónes de euros en dos mil dieciocho seguridad gestionará un presupuesto de seiscientos cuarenta millónes de euros con un incremento de cerca de quince millónes de euros las partidas más destacadas serían los gastos de personal que ascienden

y las aportaciones a la academia de publicidad de quince millónes de euros a su vez medio ambiente política territorial

y ha experimentado un incremento de catorce millónes respeto al año dos mil diecisiete se recupera un impulso a las inversiones medioambientales y se refuerzan las dotaciones para la gestión medioambiental a través de ihobe y ura además de incrementa en ocho millónes de euros la dotación para vivienda para garantizar el derecho subjetivo de acceso

con ciento diecisiete millónes de euros este año dos mil dieciocho

con cuarenta y cinco millónes de euros y también se incrementan los presupuestos de emakunde y el instituto gogora

de cinco coma cinco millónes hasta un presupuesto de ciento dieciocho millónes de euros

y política lingüística crece un tres por ciento hasta los doscientos cincuenta millónes de euros e incluye una dotación adicional para e i te be

y para las ayudas a las matriculas en euskera superior a los dos millónes trabajo y justicia manejará doscientos nueve millónes de euros y turismo comercio y consumo incrementa el presupuesto en un dos coma nueve por ciento con una cuantía superior a los treinta y ocho millónes de euros

estas son en definitiva las principales magnitudes y características del proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil dieciocho que se complementan con sus sostén normativo es decir

que aun siguiendo la estructura normalizada durante los últimos años aporta como novedad más significativa una primera relectura

a las políticas de promoción económica industrial e internacionalización en el gobierno vasco ello viene representado por los cambios de

de la sociedad para la transformación competitiva de euskadi y la definitiva puesta en marcha presupuestaria y real de la agencia vasca de internacionalización cuyos presupuestos se aprueban ello resulta coherente con la planificación estratégica

en definitiva con una orientación estratégica a través de su inserción en un horizonte de medio plazo y su vinculación con los objetivos

y dicho esto paso a abordar la última parte de esta presentación que se refiere a una descripción crítica de las negociaciones con los grupos parlamentarios para proceder a la búsqueda de una mayoría que permitiera un acuerdo para sacar adelante

consciente de la posición parlamentaria del gobierno y de los grupos que los sustentan hemos tratado

con los grupos de la oposición con el fin de procurar su aprobación por esta cámara como el pasado mes de marzo para con los presupuestos del año diecisiete

con algunos hemos encontrado algunas aproximaciones con otros

pero sobre todo de orden político hemos intercambiado nuestras ideas

grupos que no coincidían con el proyecto de presupuestos y aunque parecía que podían abrirse caminos de entendimiento en los encuentros que han tenido lugar lo cierto es que por razones extrapresupuestarias en ambos casos he de decir que no ha sido posible alcanzar acuerdo alguno en mi opinión

esas diferencias ya que cada cual afianza su postura en este contexto

su personalidad por el partido popular también hemos conversado y negociado

por espacios fiscales que tienen que ver con los ingresos presupuestarios de ejercicios venideros y sobre los que no volveré en esta presentación por resultar conocidos y redundantes hemos

en desarrollar políticas sociales dirigidas a la mejora de nuestro tejido económico a la salud al emprendizaje a la conciliación de la vida familiar y laboral y hemos coincidido en que en esta situación es bueno que haya unos presupuestos en estas condiciones llegados a este punto quisiera subrayar la predisposición al diálogo y al acuerdo del grupo popular que ha contrastado prioridades debatido consensuado enmiendas con el gobierno y ha generado los apoyos suficientes para su aprobación

pasado podemos decir en definitiva que este presupuesto es un presupuesto equilibrado

que mejora la aportación del gasto público a la economía de euskadi y que resultará importante para estabilidad y solidez de nuestro tejido productivo sin descuidar de ninguna manera el sistema vasco de bienestar y protección social aurrekontu orekatua

lehendakari jauna los parlamentarios de ezker anitza izquierda unida vamos a defender la enmienda a la totalidad de nuestra coalición elkarrekin podemos una enmienda a la totalidad que centra las prioridades del gasto público en los servicios realmente públicos frente al modelo del gobierno de trasvase de recursos a través de conciertos queremos una estructura pública fuerte y también autosuficiente defendemos una enmienda a la totalidad que pretende crear empleos frente al modelo del gobierno que pretende incentivarlos para que el mercado los cree

una enmienda a la totalidad volcada en las zonas donde viven las clases populares que peores condiciones de vida tienen no puede ser que en este país haya una diferencia

entre barrios y comarcas trabajadoras y barrios y comarcas acomodadas un ejemplo podría ser la diferencia que hay entre sestao y las arenas

los parlamentarios de ezker anitza izquierda unida defendemos un modelo distinto

en sus diferentes partidas no solo por lo tanto porque tenemos un modelo distinto de gastos públicos sino también porque tenemos un modelo distinto sobre los ingresos públicos la fiscalidad para nosotros ingresos y gastos no se pueden separar defendemos una actuación planificada

y cómo queremos gastar para definir qué ingresos necesitamos y sobre todo qué tipo de fiscalidad planteamos en el debate de presupuestos del año dos mil diecisiete

se hartaron de recriminarnos que fiscalidad y presupuestos eran dos cosas diferentes que no se podían mezclar nuestra coalición planteó la necesidad de una reforma fiscal

entre las rentas del capital es decir lo que pagan los beneficios de las empresas respecto a la del trabajo es decir lo que pagan las y los trabajadores el pnv y el partido socialista de euskadi no solo se negaron a hablar de la misma

lo repitieron ustedes hasta la saciedad era nuestra opinión

no ha pasado ni un año y nos encontramos con que estos presupuestos los del dos mil dieciocho se presentan con el respaldo de una reforma fiscal pactada con el partido popular dónde queda ahora el argumento de que no se puede hablar de fiscalidad de los presupuestos dónde queda el ahora no toca ahora toca presupuestos y no fiscalidad eso sí la reforma fiscal acordada con el partido popular no pretende reducir la diferencia entre lo que pagan las rentas del capital y las rentas del trabajo al contrario

privado manteniendo por supuesto el alto porcentaje que pagan las y los trabajadores para nosotros es evidente la hipócrita doble vara de medir del gobierno y de los partidos que los sustentan con la izquierda

pero con la derecha sí si la coalición elkarrekin podemos quiere hablar de fiscalidad para negociar los presupuestos están mezclando cuestiones que no tienen nada que ver y no se puede negociar

es la derecha del partido popular la que quiere negociar una reforma fiscal a cambio de su apoyo a los presupuestos entonces estamos ante un planteamiento legítimo que debemos atender la conclusión para nuestro grupo es clara con el partido popular sí pueden ustedes negociar la fiscalidad porque sus modelos no son tan distintos el modelo del gobierno pnv pse está demostrando estar más cerca del modelo del partido popular que del modelo compartido por equo ezker anitza izquierda unida y podemos pero esos acuerdos con el partido popular

son impopulares por eso el año pasado sus asesores acuñaron el término

podemos en la negociación había que trasmitir que se llegaba a acuerdos con el partido popular

imposibles que obligaban al gobierno a mirar al partido popular una de esas cuestiones supuestamente imposibles era una reforma fiscal estamos comprobando ahora este año

lo era simplemente porque el gobierno no quiere una reforma que meta mano a las rentas del capital y que pueda molestar a confebask en definitiva

lo que en ezker anitza izquierda unida hemos llamado la troika vasca

nosotros vamos a defender una enmienda a la totalidad pensada para una reforma fiscal al servicio de la mayoría social trabajadora del país que es la que madruga y levanta el país todas las mañanas

legebiltzarkideok hoy para hablar

lo primero no sé si dirigirme al gobierno si dirigirme al lehendakari igual debo hacerlo al partido popular o al señor alonso así que permítame

al señor alonso al que le voy a felicitar porque habéis vuelto a conseguir algo verdaderamente

vuestros presupuestos unos presupuestos que están hechos a la medida de vuestro partido y de vuestros intereses

hubieras proyectado vosotros mismos estos presupuestos desde el comienzo

permítame también que les dé el pesame a todos aquellos y aquellas que creemos que este país se merece otra cosa y que además curiosamente somos mayoría pero bueno a groso modo yo voy a valorar los presupuestos

el primero el límite de gasto que se señala este límite se aprobó en julio en madrid

de los diputados a instancias del gobierno del señor rajoy un techo de gasto aprobado y apoyado por el pnv que hoy limita la posibilidad de unos presupuestos verdaderamente expansivos en euskadi el segundo

unos ingresos que son consecuencia directa de la política fiscal y que

que se va seguir en euskadi en los próximos años si no lo remediamos

va a ser la del partido popular y la de la rebaja de los impuestos a la patronal y el tercero las prioridades de gastos pues al final es lo que importa cuando se elabora un presupuesto

las políticas de empleo son unas cuentas que son cicateras

y ramplonas en políticas de igualdad entre mujeres y hombres pero más aún además

sin lugar a dudas señores del partido popular pueden sentirse orgullosos porque hoy no se aprueban los presupuestos del gobierno sino los presupuestos del partido popular

en la imposición de sus políticas de austeridad y antisociales en euskadi

en la ciudadanía vasca tiene más poder que nunca gracias a estos tejemanejes del pnv y a su muleta el partido socialista

mandan sus políticas fiscales sus políticas de austeridad sus recortes encubiertos y manda su prioridad por el abandono de los servicios públicos y el trasvase de recursos de toda la ciudadanía al sector privado

una ciudadanía mayoritariamente progresista como la vasca que va a ver cómo las políticas fiscales más regresivas de las últimas décadas

en el mismo momento en el que arrecian las huelgas en sanidad y en educación

cómo se regalan más de diez millónes de euros a colegios y hospitales privados

siguen sin poner recursos suficientes encima de la mesa

una grave crisis en la que el empleo es más precario que nunca este gobierno pasa de largo del tema

ahora me va a permitir que me dirija a usted señor urkullu como

de gobierno que saca adelante estos presupuestos

si de verdad cree que sus pactos con el partido popular son buenos para euskadi

se pueda justificar en nombre de la estabilidad si de verdad va a ser capaz de afirmar

que hoy el partido popular y sus políticas no están más fuertes que nunca en euskadi gracias a sus pactos pero sobretodo de verdad

que con estos presupuestos en nombre de la estabilidad pueden mirar a la cara a los miles de trabajadores y trabajadoras

o que lo ven peligrar o a la gente que cobra la rgi y que ve cómo se mantienen los recortes

que piden que sus hijos no den clases en barracones o se hagan reparaciones mínimas a los profesores y profesionales de la sanidad que están en huelga y protestan pidiendo más inversión en la educación pública o en osakidetza o al cincuenta por ciento de esta sociedad y decirle que estos presupuestos apuestan por la igualdad yo creo que la respuesta es que no

pueden codearse cómodamente con la patronal con confebask con los colegios del opus y con la sanidad privada

pero estos presupuestos no están dirigidos a la mayoría de esta sociedad porque saben ustedes perfectamente que estas cuentas deberían de ser muy diferentes

que estas cuentas que ustedes ya han negociado desde hace mucho tiempo con el partido popular y no

en vano el señor rementeria hace mucho ya en londres sobre cuál era su propuesta fiscal no cumplen con las necesidades de amplísimos sectores sociales en euskadi

que estos son los mayores presupuestos de verdad lo cree señor urkullu

no lo son para las políticas de igualdad no lo son para las políticas de empleo y no lo son para la educación pública

sin duda alguna la sanidad privada esta que da palmas de alegría igual que los colegios privados

también tienen contenta a la patronal con ese aguinaldo en forma de rebaja de impuestos

tienen ustedes a todos los sindicatos en contra a todos sin excepción en contra de sus rebajas fiscales a la gran patronal en contra de las políticas educativas en contra de las políticas sociales en materia de la rgi pero de verdad esperaban otro resultado de estos negocios con el partido popular de verdad se esperaban aplausos

que no estuviera la mayoría de este país en contra de las políticas antisociales y regresivas parece mentira pero hoy en euskadi con estos presupuestos del partido popular se van a destinar trece millónes de euros

y se va a destinar esa millónada mientras ustedes siguen sin invertir suficiente en educación pública con estos presupuestos la inversión en la educación pública será menor que la del año dos mil once en plena crisis y si estas cuentas se van a aprobar

le importa poco la educación pública y que además que lo de sus políticas

este gobierno tiene previsto según sus propios datos los propios datos que aparecen en sus presupuestos destinar a igualdad el cero coma once del presupuesto

fíjese que era bastante fácil incrementarlo solo tenía que haber utilizado los diez millónes adicionales que les ha sacado al partido popular para la sanidad privada y para colegios privados con eso era suficiente para aumentar este presupuesto

sé que les molesta pero si ustedes tuvieran un compromiso sincero con la igualdad

no es una prioridad la sanidad pública y tampoco son la prioridad las políticas sociales un dato esclarecedor los departamentos de empleo el departamento de trabajo

de todo su gobierno un cero coma siete por ciento y un cero coma cuatro por ciento respectivamente pero saben algo de estas cuentas que es aún más grave si cabe

que estos presupuestos no aportan nada en materia de empleo que siguen los mismos lineamientos

pero ninguna apuesta nueva ningún incremento significativo ninguna reorientación de la política de desarrollo económica y política industrial que hace aguas ustedes dicen que han apoyado recientemente a varias empresas

ni qué tipo de apoyo ni qué tipo de intervención han tenido cuando les pedimos que nos concreten empresas empleos mantenidos

escurren el bulto cual estudiante que no ha hecho sus deberes pero es más es que incluso los sindicatos todos todos los sindicatos están diciendo que su apoyo es nulo o residual en los diferentes casos que todos conocemos

y ese dinero de todos y de todas sale de estos presupuestos de los presupuestos anteriores y de los que estamos tratando aquí dígannos qué ha pasado con cegasa qué ha pasado con fagor qué está pasando con vicrila qué ha pasado con cel

qué va a pasar con el grupo alfa en eibar qué pasa con las ayudas y prestamos que salen de estos presupuestos

con decenas de empresas en crisis y miles de trabajadores y trabajadoras que ven peligrar su empleo

en qué consiste su buena gestión en qué consiste presupuestar recursos insuficientes

pero sobre todo lo que está claro son dos cosas la primera que estos no son

y que no son los únicos presupuestos posibles no solo es deseable es que era posible presentar otros presupuestos era posible señalar otras posibilidades igual que era posible contar con otro techo de gasto

otras prioridades hoy en euskadi era posible pactar una reforma fiscal con el conjunto de fuerzas progresistas y agentes sociales

y progresiva sino que sobre todo nos permitiría sin afectar a la recuperación económica disponer de mayores recursos para mantener y mejorar nuestros servicios públicos

esta misma semana en esta misma cámara se va a plantear una agenda fiscal alternativa

pensada para mejorar los ingresos para incentivar la economía y el empleo y hacer de la vasca una sociedad menos desigual esta semana vamos a intentar sinceramente que la rebaja fiscal del pp no siga adelante vamos a intentarlo con honestidad

al menos por las que tienen un mínimo de sentido social y estas bases no son otras que las de converger con europa en fiscalidad en presión fiscal no se trata de nada revolucionario en sí mismo aunque vista la deriva en que se ha embarcado el partido nacionalista vasco y el pse con el pp al frente del timón del barco

de verdad queremos que se sumen y que apoyen esta agenda fiscal alternativa

en beneficio no de ninguna sigla de ningún partido sino en beneficio de la ciudadanía vasca que nos han votado

y también son posibles otras alternativas durante estos meses atrás y los hemos expuesto con claridad primera y máxima prioridad el empleo

para que cuenten con recursos suficientes para ser eficaz y planes de choque en las comarcas más afectadas por la crisis

muy en serio las diferencias que se están acrecentando entre unas zonas y otras del territorio ahora mismo existe una euskadi a dos velocidades en muchos sentidos y una cada vez más evidente es el de aquellas zonas como enkarterri margen izquierda

bajo deba que lejos de no salir de esta crisis están siendo especialmente

buena parte del empleo que se está perdiendo o que está en riesgo

en estas zonas se trata de comarcas que tienen índices de paro registrados muy muy por encima de la media

y en que las que además muchas de esas empresas en crisis eran las que sostenían buena parte del entramado económico son zonas como la margen izquierda con una industria auxiliar muy dependiente de empresas como la naval y se trata de comarcas especialmente abandonadas por las instituciones

o estas son absolutamente ineficaces es momento de atender esta sangrante e injusta situación que se está dando en euskadi

de tantas como dificultades tienen miles de personas y familiar en euskadi

pero hay otra que no hay otra y que no es precisamente pequeña que sigue en paro que sigue con empleos precarios o que depende de prestaciones sociales cada vez más estigmatizadas y cada más criminalizadas y ahí hay otro gran ámbito de priorización

que podría haberse visto en estas cuentas pero no ha sido así hoy el recorte de la rgi se mantiene

se mantiene a pesar de que ustedes hablen de los mayores presupuestos de la historia

del mismo modo que se puede mejorar la educación pública una educación pública que ve como la inversión que hace este gobierno en relación al producto interior bruto sigue desplomándose años tras año que ve como no se invierte en nuevos centros

que ve como en la euskadi cuatro punto cero que tanto le gusta a este gobierno se da clase en barracones

no solo es deseable es que era posible presentar otros presupuestos y presentar otras prioridades ustedes llevaban mucho tiempo

llevaban mucho tiempo a pesar del sapo que se han tenido que tragar el señor azpiazu y la señora mendia

sabía muy bien lo que decía y por qué lo decía y esto fue en mayo pero saben que es lo más curioso

que son ustedes rehenes de sus propia estrategia rehenes de los pactos endiablados

corrupto centralista como es el partido popular del mismo modo

a pactar con quien en principio es su némesis con esa derecha

que nunca son de progreso y que nunca son por el bienestar de la ciudadanía siempre son razones de estado o de estabilidad institucional las que acaban haciéndoles tragar sapos como rebajas fiscales presupuestos antisociales y regresivos o directamente contrarios a su programa electoral pero todo sea por mantenerse en el bote de unos gobiernos en los que ustedes

sí buenos días gracias presidenta el grupo socialista votará en contra de la enmienda de elkarrekin podemos porque

prometida de la que nos han hablado porque esa tierra prometida de la que usted ha estado hablando señor martínez no es real y el grupo socialista va a votar sí a que haya recursos suficientes para garantizar los servicios públicos para extender los derechos sociales

de calidad e innovador y vamos a votar sí a los acuerdos entre diferentes vamos a votar sí

hace un año que gestionáramos por eso vamos a oponernos a las propuestas maximalistas a las que temen mancharse de consensos con otros

a las que miran el titular de mañana en lugar de pensar

mi primera reflexión fue la de pensar que ustedes se habían perdido alguna página de esta legislatura y de ahí su análisis y el calificativo un proyecto continuista de los presupuestos dos mil diecisiete porque ustedes no han tenido en cuenta por lo que se ve que los primeros presupuestos los de hace nueve meses en un acuerdo de gobierno firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi en un programa de gobierno y en un programa marco por el empleo y la reactivación económica y esta estabilidad en las acciones políticas que otorgó aquel presupuesto dos mil diecisiete

en este nuevo proyecto con mejoras sin duda pero no con transformaciones radicales que no hiciesen reconocibles los objetivos que ya habíamos pactado en el año dos mil diecisiete

de su planteamiento global cuando en elkarrekin podemos no han hecho ni una sola enmienda a la totalidad ni al plan de industrialización dos mil diecisiete dos mil veinte

ni al plan de salud ni al plan de adicciones ni a ninguno de los planes que hemos tratado en este parlamento

de este gobierno dicen ustedes señoras y señores de elkarrekin podemos que los presupuestos dan respuesta a las preocupaciones del gobierno pero no a los retos que enfrenta

es hacer demagogia y populismo sin ninguna base porque este gobierno sí tiene un compromiso este gobierno sí tiene un pacto con acciones concretas

a ayudar a las empresas en crisis a ayudar a las empresas que no están en crisis a mitigar la desigualdad económica y social a impulsar los servicios públicos a ampliar y extender derechos y también a luchar contra la violencia machista porque los socialistas influimos

en la pasada legislatura lo hicimos desde la oposición en esta estando en el gobierno están ustedes en su legítimo derecho de quedarse como lo han hecho en la comodidad de sus escaños señoras y señores de elkarrekin podemos

su posición porque decenas de miles de vascos y vascas pensaron que ustedes podrían contribuir a sumar fuerzas para orientar las decisiones de nuestras instituciones

y esas personas constatan hoy una vez más como en cada momento importante que ha tenido esta legislatura corto recorrido ustedes vuelven a renunciar a hacer política y tenemos que ser los socialistas vascos quienes con nuestra presencia en los distintos gobiernos garanticemos la prioridad de la agenda social vasca

es la que refleja y la que se refleja en estas cuentas que a pesar de ustedes van a salir adelante en este proyecto presupuestario para el año dos mil dieciocho está la agenda de más de sesenta mil familias que no consiguen salir del bache

en este proyecto está la apuesta por ofrecerles oportunidades de construir una vida sin dependencia de la solidaridad evitando la cronificación de su situación pero ustedes no lo quieren ver está la apuesta por la lucha contra el fraude laboral no lo quieren ver en el proyecto está la oportunidad para que mil familias más puedan tener un techo bajo el que vivir gracias al reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda y su extensión a otros colectivos en estos presupuestos hay una oportunidad para que a cerca de dos mil familias no les corten ni la luz porque no puedan pagarlo pero ustedes no lo quieren ver en las cuentas hay una nueva apuesta por apoyar a las empresas para que generen empleo y para que ese empleo sea

a tiempo completo atajando uno de nuestros lastres de nuestros grandes lastres la temporalidad y la precariedad

de inspectores de trabajo que luchen contra ese fraude está también el compromiso de mejorar los planes de prevención y seguridad en el trabajo está la apuesta de quienes creemos en la innovación como motor de la transformación tecnológica que vivimos y por eso incrementamos incluso por encima del cinco por ciento que ya comprometimos los socialistas en la pasada legislatura

sin elkarrekin podemos significan también una puerta abierta una oportunidad a quienes llevan preparándose para tener un empleo en las administraciones públicas una puerta abierta y una oportunidad para que trece mil quinientos personas puedan estabilizar sus puestos de trabajo

a la función pública una oportunidad para ese relevo generacional del que ustedes hablan en su enmienda a la totalidad y que tanta falta hace en nuestra sanidad en nuestra educación

sigan el camino de la recuperación paulatina de su nivel adquisitivo todo eso está en estas cuentas todo eso está en estos presupuestos para dos mil dieciocho

podían haber hecho otra lectura de los presupuestos y de la situación política también pero es difícil explicar que hace tres semanas nos pusieran sobre la mesa modificar el destino de ciento veinte millónes de euros y que les dijéramos

y que hoy defiendan con ardor la devolución de unos presupuestos que simularon que simularon querer acordar porque sí ustedes lo justifican

más igualdad más inversión en centros educativos y nosotros los socialistas vascos y el gobierno vasco les dijo que estábamos de acuerdo pero ahí se quedaron ahí decidiendo no negociar en la pancarta no negociando pueden vestir este debate señoras y señores del elkarrekin podemos como ustedes

pero una enmienda a la totalidad supone o debiera suponer en la práctica política algo más

debería suponer que se tiene una propuesta alternativa y la de ustedes sencillamente ni está ni se la espera

los doscientos cincuenta de los que hablan ahora en sus enmiendas parciales porque suman en un lado restan en otro

es un uno por ciento del total presupuestario un uno por ciento nunca puede ser una alternativa ni un modelo alternativo y no es un argumento de peso para intentar aparentar que hay otro modelo económico u otro modelo de país

no es motivo alguno y nos están dando otra información añadida además porque para los presupuestos en vigor estos del dos mil diecisiete ustedes se proponían en marzo allá por marzo cambiar mil seiscientos millónes de euros doce veces más

enmienda a la totalidad y haciendo cuentas así a groso modo resulta que elkarrekin podemos

solo en este primer año de gobierno en el que participamos los socialistas esas necesidades se han reducido un ochenta y tres por ciento teniendo en cuenta sus enmiendas

no me los invento están registrados a través de las enmiendas y en su enmienda

y en marzo justificaban la enmienda a la totalidad que presentaron a los presupuestos para dos mil diecisiete en el cambio del catorce por ciento del proyecto presupuestario durante su tramitación pasaron de cuatrocientos sesenta y siete enmiendas

catorce enmiendas parciales el cero coma uno por ciento del total y respaldaron la mayoría de las enmiendas que propuso el partido popular en la comisión de hacienda y presupuestos primer baño de realidad presupuestario que se tuvieron que dar claro que también partieron de un cálculo de ingresos un tanto desbaratado hace un mes intentaron deslumbrarnos con una propuesta fiscal que nos aportaba

de un plumazo han vuelto a plantearlo ahora y además le añaden otros quinientos millónes de euros al año por la acción de la lucha contra el fraude fiscal que plantean

concreta a ningún debate en este parlamento ni la contrastaron con nadie en esta cámara pero sí les sirvió para algo para dar una rueda de prensa para tener un titular más hoy piden un pleno monográfico y lo tendremos pero otros mientras ustedes hacían esas trampas otros estuvimos haciendo dos cosas

las cifras de la recaudación y de los impuestos una a una analizando su evolución la de cada impuesto en cada tramo desde que hicimos la reforma

llegar a un acuerdo sobre las propuestas porque esto de acordar esto que parece así como muy raro para algunos es un paso que algunos se les olvida pero que es absolutamente necesario cuando se necesitan mayorías y muy sano cuando no se necesitan

hemos conseguido llegar a un acuerdo eficaz para la ciudadanía vasca que nos permite garantizar una suficiencia de recursos

que permite además extender derechos sociales y además hacer viable el progreso económico en euskadi para que haya más y mejor empleo sin sacar conejos

con realismo y siendo prácticos y posibilistas

que no saben o no entienden los socialistas vascos cuando pedimos la confianza a la ciudadanía nos comprometimos a trenzar acuerdos con cualquiera que quisiera compartir nuestros objetivos es lo que hacemos cada día en esta cámara lo que hacemos en cada pleno y en cada comisión lo que hacemos con todos los grupos de forma reiterada también con elkarrekin podemos

en cifras en partidas en gastos concretos y somos realistas y consecuentes con esa realidad porque llevamos ya un trecho de legislatura recorrido como para darnos todos cuenta

que lo que hoy a once de diciembre de dos mil diecisiete décimos es exactamente lo mismo palabra por palabra que lo que dijimos el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis en el primer pleno de investidura y lo que también manifestamos en el pleno de política general en el mes de septiembre los socialistas vascos sí queremos

los socialistas sí queremos que la ciudadanía a la que representan se sienta reflejada en estos presupuestos para dos mil dieciocho y también en sus políticas pero si ustedes renuncian a la política renuncian a la negociación los socialistas no vamos a hacer su trabajo y no lo vamos a hacer por elkarrekin podemos nosotros no estamos en este parlamento ni en el gobierno

campaña electoral porque todo tiene su momento y este es el momento de estar para solucionar los problemas de todos y todas piensen como piensen

de quienes también hemos estado en la oposición los y las socialistas sabemos el valor que tiene sentarse aquí y batirse el cobre para cambien y mejorar la vida de la gente y resolver sus problemas

mucho recuperar un clima de tranquilidad en el que la ciudadanía se sienta reconocida y no se vea excluida y no vamos a tirar por la borda ese esfuerzo por irnos mañana

unos cuantos titulares de periódicos por eso los socialistas estamos a otra cosa no es que el gobierno necesite numéricamente acordar que también

y a nadie absolutamente a nadie los vascos y vascas nos concedieron

la posibilidad de que nuestras ideas por muy buenas que nos pareciesen fuesen las que salieran adelante sin el concurso de los demás y cuando se plantean alternativas estas tienen que ser reales y tienen que ser posibles y por eso por estos argumentos vamos a votar en contra
de su enmienda a la totalidad nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak

aipatzen duzuena behintzat el congreso en la sesión de hoy

la propuesta del gobierno sobre la figura difundida públicamente como techo de gasto

aunque tengo que insistir en que lo que se va a votar son los objetivos de déficit y de la deuda y no el límite de gasto y el techo de gasto que compete exclusivamente al gobierno establecer el límite el techo de gasto compete exclusivamente al gobierno martínez jauna

se ha abandonado la protección social en el ámbito de la salud se ha abandonado el sector público

políticas de igualdad ramplonas que hay que hacérselo

servicio de acompañamiento jurídico terapéutico en el ámbito judicial para las mujeres víctimas de violencia de género se va a incrementar la partida destinada a asistencia jurídica gratuita se va a inaugurar este mismo mes un punto de encuentro familiar en las ope previstas consolidarán las plantillas destinadas en los juzgados de violencia contra la mujer gizarte gaietako departamentua

y le voy a poner unos ejemplos claro porque vamos a utilizar lo que de esa herramienta

y lo que luego realmente que todas las políticas estén realmente impregnadas desde la perspectiva de género vamos a ver por ejemplo

y políticas sociales por ponerle un ejemplo tenemos

donde pone cuánto se destina vemos que efectivamente se hace un esfuerzo grande pero no se incluye por ejemplo

pero en su convocatoria en su convocatoria dice incorporación de la perspectiva de género

deberán tener en cuenta todas las necesidades específicas de mujeres si vamos a la convocatoria de concesión de subvenciones para impulsar el ámbito local la red de equipamientos juveniles

no se incluye el presupuesto correspondiente pero si vamos a su convocatoria veremos que también

si nos vamos a salud vemos que si ustedes analizan

pero por ejemplo no está incluida la prevención comunitaria de adicciones donde se dice en los criterios de adjudicación se tendrá en cuenta

cuando su diseño ejecución evaluación se toma en consideración diferentes situaciones condiciones y necesidades de mujeres y hombres si nos vamos al departamento de cultura

estos programas veremos que en el programa de organización de festivales de las diferentes áreas culturales uno de los apartados que se tiene en cuenta es porcentaje de mujeres en los jurados si nos vamos a la convocatoria de creación gráfica comics novelas gráficas

ilustradoras si nos vamos al departamento de desarrollo económico e infraestructuras también vemos la convocatoria para la concesión de subvenciones a las asociaciones ganaderas de razas puras de la comunidad autónoma de euskadi uno de los criterios

que se valoran en quince puntos si vamos a educación exactamente igual esto es mirar esto es hacer un análisis más allá de datos que nosotros podemos tener impregnar todas las políticas impregnar todas las políticas esto es hacer política de igualdad y eso es lo que ustedes

con lo que la herramienta ofreciendo mucho ofrece estamos avanzando pero tenemos que analizar con más criterio pasatuko gara industriaren

exclusión y desigualdad por la puesta en marcha hace más de veinticinco años del plan de lucha contra la pobreza origen den actual sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social

los diferentes indicadores que miden la desigualdad sitúan a euskadi como una de las sociedades menos desiguales en el contexto europeo

hay que reconocer el esfuerzo que el país vasco está haciendo en el sistema por poner algunos ejemplos y tomando los datos del informe sobre las rentas mínimas

el país vasco en dos mil quince el gasto es del treinta y cinco coma noventa y dos por ciento del total en las rentas mínimas el gasto anual por titular del país vasco es de seis mil setenta y cinco y además conviene advertir

en sanidad en educación en servicios sociales el país vasco es la comunidad autónoma que más gasta por habitante o está entre las que más gasta es decir no es una excepción el caso de la renta de garantía de ingresos eta hori no dice la derechona

zer den gura duguna atención sanitaria de calidad y universal apoyar

sobre las desigualdades por razones uno socioeconómicas dos de género y tres de diversidad funcional baina arlo honetan minutu bat daukat eta zuen

amaituko dut eta decía el compañero uria en comisión vaya pasta que tiene entre las manos consejero

nos vamos a colocar entre lo que yo conozco en el más alto nivel per cápita del estado en las próximas valoraciones y nos vamos aproximando a lo que hablábamos de incrementar el uno por ciento

al promedio de la unión europea quince vaya satisfacción terminaba el compañero uria ulertzen duzu zuen osoko zuzenketaren

se tendrá en cuenta no garantiza la realización se tendrá en cuenta no es un compromiso claro ante la aplicación de políticas de igualdad en este tipo de convocatorias

en el caso de que su gobierno en las últimas jornadas organizadas por la spri ponía la gestión de empresas como siemens gamesa y qué ha pasado después que esta empresa anuncia un ere del que una vez más

una vez más y por ejemplo la señora tapia es la última en enterarse

dicen que quiere reducir la elevada temporalidad de los contratos y la parcialidad no deseada el desempleo juvenil que es elevado de personas mayores

ni mención ni crítica ni posicionamiento frente a la normativa laboral que afecta a las políticas de empleo

que el gobierno suyo es competente no se plantea ninguna alternativa a las reformas laborales que tanto han precarizado las condiciones laborales señora corcuera

dígame usted

en qué cambiarían estos presupuestos si el partido socialista no estuviera en el gobierno porque yo le digo que absolutamente en nada una aclaración más técnica los planes no se pueden

y nosotros somos el grupo que más enmiendas parciales ha presentado a los planes que se han presentado aquí el que más cambios ha presentado ante esos planes

y yo le pregunto cree usted que trescientos millónes

decir le pude plantear a las familias de enkarterri a las familias

que las inversiones que nosotros proponemos en las enmiendas parciales no son nada que no modifican nada que no cambian nada le parece que son desestimables

ese desprecio le hace a las propuestas que hacemos desde luego no es nuestra responsabilidad

nuestra responsabilidad precisamente es señalar las carencias que tienen estos presupuestos y como lo hemos hecho y como les duele precisamente es

pretenden atacarnos a nosotros que por eso también

y ese tipo de calificativos que en realidad no tienen una definición

y más dañino para euskadi que la demagogia es el cinismo el cinismo de decir por ejemplo que estos son los presupuestos más grandes de la historia

que es una prioridad para el gobierno en el que ustedes están

a capa y espada acuerdos con el partido popular acuerdos por ejemplo o reformas fiscales ante las cuales hace un mes decían categóricamente que no iban a bajar el impuesto de sociedades

y eso nos hace daño pero bueno como he comenzado mi intervención felicitando al partido popular y al señor alonso por haber conseguido con tan pocos escaños en este parlamento condicionar la política presupuestaria y fiscal pues desde luego

que tiene que soportar estos presupuestos y está claro que hoy

hoy gracias a los pactos que hemos visto en euskadi hay un pp más fuerte que nunca

déficit sus rebajas a la patronal sus políticas de austeridad y antisociales

pero bueno como he dicho al igual que felicito al partido popular

este tipo de políticas en euskadi y

no es inevitable que en esta cámara existe

que vamos a presentar para una agenda fiscal alternativa no vamos a cejar en nuestro empeño

de mercancía averiada y de malas políticas que se están importando

durante muchos años en esta cámara se votaban enmiendas a la totalidad de los presupuestos y eso era lo que se votaba pero hace una década se cambió el reglamento

precisamente para que se votara no una enmienda

político sino la voluntad de una parte o de la mayoría de solicitar la devolución de unos presupuestos aunque también se pueden presentar alternativas al presupuesto

pero ninguna alternativa nunca una propuesta alternativa y desde entonces si yo ya sé que les molesta pero respeten un poquito desde entonces

en la que un gobierno tuvo que guardarse el proyecto en el cajón fue hace cuatro años y medio ustedes no estaban pero sí estábamos los socialistas vascos

y presentamos una alternativa real con números tasados sobre ingresos renunciamos en aquel entonces a presentar enmiendas parciales y conseguimos que de un proyecto que presentaba recortes por valor de mil quinientos millónes de euros

de incrementar ingresos y que se tradujera en nuevas políticas sociales por valor

así hay que hacer las cosas no como las hacen ustedes y ahora no hay ninguna alternativa a este proyecto que haya presentado elkarrekin podemos

en salud en educación en renta de garantía de ingresos en vivienda en empleo en planes industriales y en innovación

alternativa a eso que es lo que estamos debatiendo hoy aquí piden más dinero para programas lo que no supone ni un cambio en el modelo presupuestario ni

económico ni político ni social en euskadi y además de no tener alternativa tienen otro problema y es que no suman y no suman y no quieren sumar no suman porque tienen miedo

de estos quince meses por eso los socialistas nos hemos comprometido

pero también de garantizar el marco de estabilidad política que ha facilitado nuestra participación en los gobiernos sí otros partidos desdeñan y desperdician la posibilidad de influir en los presupuestos y en los gobiernos los socialistas vascos

y el consenso político para los asuntos de importancia que tenemos en este parlamento como son las reformas de la renta de garantía de ingresos la reforma de lanbide los planes de zonas desfavorecidas la ley de transparencia la ley del sector público y no desesperamos que lo sepan desde que ha salido usted señor martínez a esta tribuna ha habido cuestiones como el hecho de que

únicamente preocupados por las zonas más desfavorecidas y por qué

de enmiendas a la ponencia que tenemos en marcha si tanto urge haberse dejado de ampliación de plazos de enmiendas porque estamos todos preocupados

y seguimos esperando para que esa ponencia tenga su conclusión ustedes tienen un problema de titulares cuando dicen que quieren la convergencia con europa en materia fiscal nosotros también nosotros también pero no se olviden que en el impuesto de sociedades y el tipo nominal en europa

y es el de la reforma fiscal que tenemos acordada y cómo cambian

todo eso está puesto aquí y esta es la reforma que los socialistas hemos acordado porque era la posible la factible y ustedes se alejaron de esa negociación

están en su legítimo derecho pero luego no protesten porque vienen otros a acordar no protesten

además decía usted somos rehenes rehenes de nada señor martínez

usted y sus circunstancias para no haber negociado es usted el único los demás estamos libres de polvo y paja como se suele decir para entrar en una negociación sí sí ríanse lo que quieran

por eso no llegarán nunca a acuerdos ni serán influyentes para este país no lo han hecho posible

le ha dado usted señor martínez por hacer dramas plantear tragedias darnos el pesame y la gran tragedia es que ustedes no son capaces de ver el alcance de lo que debe suponer

en un momento en que se necesita el impulso de todos para salir adelante el impulso de todos para conseguir eso que ustedes plantean en su enmienda a la totalidad pero como les decía al principio

y desde el respeto a su proceso interno ese respeto que no suelen tener con nosotros les décimos con sinceridad que quedan tres años que aún queda recorrido y cuando pase este quince de diciembre y decidan cuál es su proyecto y quien lo va a dirigir esperemos que se decidan a sumar fuerzas para ofrecer en la práctica

a los problemas que de verdad tiene la ciudadanía vasca y no al ilusionismo político
al que están muy acostumbrados nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea

el análisis tanto de la enmienda de totalidad que es lo que hoy se debate como también de una visión conjunta

han presentado la conclusión que tenemos que sacar que nosotros sacamos es que en absoluto las enmiendas que ustedes presentan las parciales cambian la orientación de las políticas públicas y de los servicios públicos que pretende financiar que pretenden financiar los presupuestos que el gobierno nos ha presentado en absoluto cambian la orientación tienen una naturaleza claramente incrementalista o sea lo que hacen es ampliar algunas de las partidas que están recogidas y en algunos casos eliminar algunas con claro

con la reducciones de sueldos a cargos porque eso queda pues supongo que muy bien dentro de la sí sí

político que tanto les gusta a ustedes hacer porque resulta que aquí no hace mucho tiempo ustedes han estado defendiendo un colectivo

decían que era de los pocos colectivos obreros que tenían unas condiciones de vida dignas y los sueldos que ustedes están planteando pues serían en algunos casos doce mil euros menores que esos colectivos obreros que tenían condiciones

y en otros no por tanto eso es postureo político pero es que la política es más que estrictamente político es mucho más política

decisiones y hacer los presupuestos es establecer prioridades en un contexto

limitados con recursos escasos y recursos limitados y decir qué se pone y qué no se pone y ustedes han perdido una oportunidad ustedes han perdido una oportunidad de oro porque con

en el proceso de negociación lo mismo que ha hecho el partido popular ha entrado en la negociación ha decidido que con la capacidad que había para poder incrementar y no modificar pero sí subrayar determinadas políticas públicas que el gobierno vasco tiene en marcha ellos han dicho nosotros queremos que se subraye estas políticas en salud estas en equilibrio territorial estas en emprendimiento

más allá del postureo la igualdad diciendo diez millónes de lo nuestro para potenciar políticas de igualdad saben ustedes qué empujón le hubieran dado

diez millónes para inversiones en centros escolares públicos

a las ayudas de emergencia social en las enmiendas parciales ponen un millón más en ayudas de emergencia social lo podían haber puesto

lo podían haber incluido les llegaba para todo eso y ustedes han renunciado a todo eso por cobardía por postureo por no decir yo

supuesta en la calle todos vamos a la calle cuando llegamos a acuerdos con unos y con otros gobiernos a todos nos gustaría más seguir con nuestras propias políticas sin llegar a acuerdos con nadie pero eso es comprometerse y eso es comprometerse con las políticas públicas que uno defiende y ser consecuente y ser coherente hasta el final y decir si de verdad yo considero

en ese margen que tengo yo de potenciar determinadas políticas lo voy a hacer voy a ser responsable

y voy a reforzar ustedes han perdido una oportunidad de oro de subrayar insisto esas políticas que para ustedes tan importantes son zuen esku egon da

han renunciado ustedes a la práctica política y a

de vida de las vascas y de los vascos por discurso político

ukatu dion tokia eman diozuela euskal politikan beraz la pela es la pela ere galdetu daiteke miren si quieren se puede utilizar

y es que si ven un ave que anda como un pato nada como un pato tiene un pico como el de los patos incluso hace cuá pueden ustedes llegar razonablemente a la conclusión de que en efecto están ante un pato

si esos presupuestos plantean un proyecto de país que coincide con los del ciento cincuenta y cinco si mantienen recortes que aplauden los del ciento cincuenta y cinco

de algunos del ciento cincuenta y cinco no lo duden son los presupuestos del ciento cincuenta y cinco y no será euskal herria bildu

porque rechazar el ciento cincuenta y cinco es solidaridad con cataluña pero también

y es defensa también de la calidad de vida y de los servicios públicos porque la dependencia no solo nos impide desarrollarnos como pueblo sino que perjudica nuestra economía y nos hace retroceder y acercarnos

en lugar de ponernos en la dirección de los países más avanzados no hay que olvidar lo pernicioso social y económicamente que resultan las medidas impuestas por españa regla de gasto límite de déficit tasa de reposición reforma laboral parte de la reforma fiscal etcétera

el presupuesto del presupuesto lo destinado del pago de la deuda y del tren de alta velocidad es menor hoy que en dos mil nueve en dos mil dieciocho se destinarán nueve mil novecientos setenta y ocho millónes

el presupuesto es casi un quince por ciento inferior al de dos mil nueve y esta es la realidad

y la recuperación eta errealitate honen aurrean

que el año pasado era imposible abordar de una forma conjunta

este año se ha realizado sin problemas claro que en sentido contrario al que demandaba la mayoría de este país y la mayoría de esta cámara incluyendo a consejeros y socios del gobierno hasta hace muy pocas semanas por eso estos presupuestos son los del ciento cincuenta y cinco y los de confebask

de un mal acuerdo y semilla de malos presupuestos en el futuro hortaz txalo bat merezi zenuke azpiazu jauna benetan

si los ricos aplauden el pueblo sabe que no se avecina nada bueno

proiektu honek ez du horretan lagunduko usted mismo lo ha dicho a lo largo de este año señor azpiazu no hay grasa en la administración

la recaudación tiene que ser mayor lo ha dicho usted educación y salud no pueden seguir con presupuestos como los de hace diez años

porque no sabemos muy bien a dónde nos dirigimos diciendo una cosa y haciendo mañana la contraria necesitamos un país

y señoras y señores del partido socialista pues no sabemos si vamos a pagar más impuestos menos impuestos si van a modificar el

o en el cuarenta pero sí sabemos eso sí sabemos que tienen ustedes el aplauso de confebask la patronal les aplaudirá puesta en pie porque lo único claro

pagaran aun menos y tendrán unos doscientos millónes de euros más en el bolsillo una cantidad que ha calculado

porque oyéndoles a ustedes no hay quien se aclare unos dicen una cosa otros dicen la contraria y otros callan

señoras y señores del gobierno señoras y señores del partido nacionalista vasco partido socialista y del partido popular que estamos hablando del dinero de los

de algo muy serio por tanto como para andar con frivolidades hablamos del dinero que pagan

que aspiran a vivir en un país más digno con gobernantes serios

porque estamos hablando de doscientos millónes de euros que los empresarios dejarán de pagar y que pagaremos los demás volverá a quedar claro que este gobierno sigue mostrándose sumiso y servil con lo poderoso y siempre arrogante

un gobierno que se esconde ante los problemas difíciles como la pérdida de poder adquisitivo de los salarios las condiciones del mercado laboral

un gobierno conservador que confunde deliberadamente estabilidad con pasividad prudencia con inacción realismo con conformismo un gobierno que confunde

un gobierno que quiere sumir a este país en una autocomplacencia injustificada

en la comparación con el vecino que está peor en lugar de buscar

a los que deberíamos tener como referencia este país tiene retos importantes y urgentes a nuestro juicio

mejorar el reparto de las rentas mediante un crecimiento salarial y una política fiscal

mejorar los servicios públicos tenemos retos trascendentales pero a pesar de la propaganda no vivimos en

el doce por ciento de la población está en paro una de las tasas

por el descenso de la población activa el noventa y tres por ciento de los contratos que se firman en la comunidad autónoma vasca son temporales el treinta y dos por ciento de las personas que trabajan lo hace con contrato eventual un veinticinco por ciento de las personas

los salarios han perdido entre un ocho coma cinco y un cuatro coma ocho según la metodología de poder adquisitivo en los últimos años

y también de china más cerca de españa que de alemania el porcentaje de pib que representa el presupuesto del gobierno vasco ha pasado del quince por ciento en dos mil nueve

en dos mil dieciocho eso significa que tenemos peores servicios públicos

de exclusión social que lo haremos más tarde de un sistema educativo con grandes problemas

pasando por todas las etapas del ciclo educativo de una sanidad que retrocede de una administración minada por la temporalidad de una industria que envejece con crisis y cierres de empresas que se producen un día sí y otro

todas no se trata en todo caso de hacer catastrofismo pero sí de constatar que queda mucho por hacer y que resulta inaceptable poner la estabilidad

como si tuviéramos una realidad tan idílica que lo único que nos quedara fuera estabilizarla renunciar al cambio a los objetivos estratégicos y al compromiso

son las señas de identidad de este gobierno que habla de estabilidad para encubrir un talante profundamente conservador en el sentido más político de la palabra

y se lo comienzan a decir a ustedes desde ámbitos empresariales porque no solo existe confebask y también se lo dicen desde ámbitos académicos nosotras hemos ofrecido soluciones y lo seguimos haciendo lo seguiremos haciendo pero ustedes se niegan ni siquiera a discutir esas propuestas lo hemos visto en el proceso que nos ha traído

de nada que no fueran los presupuestos pero es que el artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución española y su perversa aplicación tiene mucho que ver con los presupuestos muchísimo y tiene mucho que ver porque deja claro quién tiene la sartén por el mango y el ciento cincuenta y cinco por eso mismo tiene mucho que ver con lo que hablamos

permite cepillarse gobiernos y parlamentos es igual que hayan sido elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas permite que el gobierno de españa intervenga cuentas incluso en las bibliotecas públicas o en las investigaciones contra el cáncer

y sin necesidad de ese ciento cincuenta y cinco ya se pueden tumbar leyes en este parlamento limitar el gasto no permitir que gestionemos nuestros propios dineros marcar el horario

no permitir contratar el ciento cincuenta y cinco es la guinda y la esencia de todo lo que nos constriñe por eso hablar del ciento cincuenta y cinco es hablar de presupuestos de cosas concretas porque el ciento cincuenta y cinco no es más que el afilado filo de la espada que día a día pende sobre nuestras cabezas

y señoras y señores del partido socialista a ustedes

en más de una ocasión sus votos han hecho posible han aplaudido y aceptado que el gobierno de españa pueda disolver un parlamento autonómico

garantía de izquierda o eso es lo que dicen últimamente se los ve de lo más cómodo reduciendo impuestos a las grandes empresas

quizás se lo recuerden en alguna casa del pueblo o en la unidad general de trabajadores quizás deberían revisar ustedes conceptos como izquierda socialismo

en todo caso tampoco deberíamos de extrañarnos mucho porque son ustedes los mismos que se aliaron con mayor oreja para

y los mismos que llegaron a ajuria enea con el apoyo del partido popular

beste kide bat izatera han elegido ustedes jugar la liga española o la copa del rey si lo prefieren o la del ciento cincuenta y cinco eroso zaudete

gracias presidenta el grupo socialista tenía algunas dudas sobre el debate de la enmienda a la totalidad de bildu

y más de lo mismo no hemos tenido en cambio ninguna duda al volver a defender porqué votamos a favor

y se sienta como se sienta ha quedado muy claro que esta enmienda a la totalidad de euskal herria bildu se sustenta en el intento de borrar del mapa político al partido socialista de euskadi se sustenta en la exclusión se sustenta en la negación del diferente

política del rival se sustenta en una tesis que para bildu empieza a ser un mantra

a los que no son como vosotros a los que no son como euskal herria bildu se sustenta en la antipolítica

éxito en europa y nuestras dudas en el debate de su enmienda a la totalidad han sido pero qué hacemos los socialistas vascos discutiendo con quienes pretenden aniquilarlos políticamente

la violencia terrorista nos ha impedido hacer posible que en euskadi haya una escuela pública sobre la que se vertebra el sistema educativo sin dar un paso atrás en esa conquista acaso no saben ustedes que incluso con esa terrible amenaza no dimos ni un paso atrás en la transformación de las ikastolas por ejemplo para que dejaran de ser un gueto

acaso no saben que incluso que antes de que le mataran un socialista

hizo posible que la sanidad en españa fuera reconocida como un derecho universal y otro socialista fue el primero que desde euskadi lo garantizo acaso no saben

otros hicimos que en euskadi fuera posible la renta de garantía de ingresos acaso no se han enterado de que les empujamos para que junto con otros grupos parlamentarios además de con el nuestro fuera posible en euskadi el derecho subjetivo a la vivienda acaso no saben que sin los socialistas la hoy euskal herria bildu

que no quieren que los socialistas gobernemos y los socialistas vascos no hacemos nos hacemos también estas reflexiones en voz alta pero quién es euskal herria bildu para decidir quién puede o no formar parte de un gobierno

miran a los suyos cuando han demostrado en cuanto han tenido oportunidad su incapacidad de gestión institucional y cuando son quienes se escabullen

por la ciudadanía cuando esta no obedece a su ideario político estas son las reflexiones señora iriarte que a los socialistas vascos nos merecen la enmienda a la totalidad de bildu y a la que votaremos en contra

ninguna alternativa ni presupuestaria ni política ni de país votaremos en contra por la incapacidad demostrada de sus autores de generar mayorías

de sus números y porque es antidemocrática en sus planteamientos bildu defiende su enmienda a la totalidad del presupuesto

específicamente cuando tuvieron la oportunidad de cambiar políticas esas que ahora tildan de continuistas y sí la izquierda abertzale tiene una inmensa responsabilidad una inmensa irresponsabilidad según se mire por tratar de hacer política desconociendo la realidad

en la vida institucional tienen una inmensa responsabilidad por sus remilgos y sus reparos a la hora de hacer pactos de país

por el bien de la mayoría tienen una inmensa responsabilidad por pensar en los intereses de quienes dirigen el sindicato más importante de este país y no en sus miles de afiliados tienen mucha responsabilidad por buscar siempre una escusa para todo y no ser participes

para la ciudadanía vasca la última innovación de este año para el dos mil dieciocho ha sido justificar

y su posición contraría en los problemas de los independentistas catalanes

a negociar los presupuestos la presencia de los socialistas en el gobierno vasco la presencia en definitiva de quienes desde euskadi desde madrid

evitar esa aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución y que los nacionalistas catalanes dinamitaran su autogobierno

entonces y ahora y nuestros compañeros catalanes del psc también los socialistas no quisimos ni la declaración unilateral de independencia ni la aplicación del ciento cincuenta y cinco ese artículo que esos mismos independentistas

están acatando uno a uno mientras bildu estaba

los socialistas vascos estábamos participando en el diseño de los planes y reformas estratégicas que pretenden transformar y mejorar la vida de la ciudadanía vasca

en la dui los socialistas plan a plan reforma a reforma

nuestra apuesta de futuro mientras bildu sigue regodeándose en el caos provocado por sus aliados catalanes a los socialistas nos ha ocupado la búsqueda de aliados en la estabilidad política que demanda la ciudadanía vasca esta es la realidad esto es euskadi señoras y señores de euskal herria bildu esto no es lo que imaginan es lo que es en definitiva un país donde algunos y algunas aunque les pese a ustedes

por conseguir suficiencia de recursos económicos haciendo que pague quien más tiene

donde aunque ustedes lo disimulen los socialistas hacemos lo que ustedes también querían y es que subiera el tipo efectivo del impuesto de sociedades lo que efectivamente pagan las empresas por sus beneficios acercando la fiscalidad por ingresos empresariales a la fiscalidad por ingresos de trabajo un país

y pide a los partidos políticos que se busquen y que logren acuerdos entre diferentes un país donde aunque a ustedes les moleste

quisieron ustedes pactar con nosotros y que nosotros los socialistas con esfuerzo y también con tenacidad hemos ido haciendo realidad como ampliar ayudas para compensar el medicamentazo ampliar la cobertura de la pobreza energética estudiar la extensión de la renta de garantía de ingresos a nuevos colectivos reforzar el derecho a la vivienda

incrementar el salario de los funcionarios volcar nuestros esfuerzos en la lucha contra el fraude laboral todo esto y bastante más lo estamos materializando los socialistas

porque a los socialistas no nos caduca la palabra dada y menos aun a los socialistas no nos caduca nuestra profunda convicción de que el mejor país que se puede construir

todos y todas y esta más allá de los sentimientos nacionalistas y soberanistas que ustedes tienen y nosotros no es la mayor diferencia que nos separa pero la mayor de todas el concepto en sí mismo y de pluralidad y aunque este es el poso profundo que recorre toda su enmienda a la totalidad presupuestaria que es una enmienda a la totalidad de acuerdos de los que ustedes huyeron

no obviaremos la mayor porque insisten en mentir para intentar simular que su apuesta presupuestaria es alternativa pretenden cambiar el destino del cuatro por ciento del presupuesto incluyendo el tren de alta velocidad cuando resulta que la cuarta parte

ustedes lo saben mejor que nadie no la pueden destinar a otra cosa porque se trata de una encomienda de gestión y es un gasto que tiene a su vez un ingreso del gobierno de su tan denostada

en el ingreso y en el gasto y ustedes sabiéndolo mejor que nadie

con las enmiendas parciales y bildu se hace trampas en el solitario y otro año más hay que decirles que eso señorías que son reiterados los informes jurídicos de esta misma casa que les dicen que eso a tener en cuenta y queda claro que si no pusieran esa cifra les quedaría aun más flojo el argumentario para venir hoy aquí a explicar qué razones hay para devolver un presupuesto como este al cajón porque pretender cambiar el destino de unos doscientos cincuenta millónes de euros

no justifican esa petición de la enmienda a la totalidad se mire

pero es más se puede estar de acuerdo o no con el tren de alta velocidad

pero pretender que haya alguien que crea que un presupuesto es regresivo antisocial y mediocre

es una debilidad preocupante para ser un grupo que lidera la oposición solo resulta interesante de su enmienda a la totalidad conocer la excusa anual para su rechazo presupuestario este año es que los socialistas vascos

planteó al gobierno vasco un documento con una condición previa para negociar

ustedes dieron prioridad a la condición sobre la negociación ustedes dieron esa prioridad y como les decía este año los socialistas estamos en el gobierno hace nueve meses en marzo del dos mil diecisiete es que había una insuficiencia de recursos económicos no se aceptaba la negociación de los ingresos y por lo tanto enmienda a la totalidad que cae en el año dos mil dieciséis ustedes presentaron al grupo socialista un listado de inversiones para ver si podríamos estar de acuerdo y les dijimos en el listado sí pero cómo pretenden financiarlo

y otra enmienda a la totalidad esa es en definitiva siempre su excusa

ustedes puedan presentar una enmienda a la totalidad en definitiva lo suyo es el no por el no y

los que niegan una actitud proactiva de este gobierno cuando vuelven a quedarse fuera de un acuerdo por anteponer intereses de partido a los intereses de la ciudadanía vasca

y concluyo a pesar de ustedes y de su empeño por la exclusión los socialistas vascos haremos

para todos y para todas y también haremos lo imposible por propiciar la estabilidad política e institucional que es lo que nos está reclamando la ciudadanía

seguiremos teniendo la puerta abierta para intentar conseguir su participación en todo lo que tenemos por delante que es mucho otra cosas será que ustedes quieran
o no puedan muchas gracias eskerrik asko

el pnv debe optar entre iniciar un diálogo y una negociación sincera para llevar conjuntamente a este país a una situación de estabilidad basada en la democracia y en la justicia social o si por el contrario prefiere seguir

si a eso unes el condicionante vamos a calificar social

o sindical del bloque sindical exógeno o endógeno me es igual el condicionante

qué posibilidades reales políticamente porque cruzar enmiendas valorarlas podemos hacer y desde luego voy a dedicar parte de mi discurso

el protagonismo que ha tenido su partido en esta negociación presupuestaria lo vimos en la foto de la firma de azpiazu y damborenea lo hemos visto cuando idoia mendia se reunía con cebek y decía que no se iba a bajar el impuesto de sociedades

porque tiene que justificar un presupuesto conservador a espaldas de la sociedad por lo que

tan a gusto en este acuerdo los acuerdos por los acuerdos bueno tienen la importancia que tienen y tienen el interés que tienen

mejorar la vida de la ciudadanía de las mujeres y hombres de este país pues me parece

no muy grande quiero terminar lo que me queda de tiempo con un dato que he leído estos días

reciente sociómetro que hemos tenido oportunidad de leer todas y todos bada datu bat benetan asko arduratu nauena eta

lo vistan como lo vistan la enmienda a la totalidad de euskal herria bildu esconde su propia frustración

desde la oposición mediante la moción de censura al lehendakari presentando una alternativa pero la alternativa que euskal herria bildu tiene porque está cuantificada hace trece meses son dieciocho votos de setenta y cinco y es mucho pero que esos dieciocho escaños y no tienen más porque no tienen con quien sumar proyecto con quien compartir estrategia

por eso no tienen tampoco la alternativa para estos presupuestos

en este debate y los presupuestos que aprobaremos a pesar de su discurso excluyente son los que van a posibilitar el reforzamiento de los servicios públicos esos que tanto les preocupa

son esos presupuestos los que van a posibilitar la extensión de derechos llegar a más gente

para que se apliquen además las políticas públicas acordadas y son los que van a posibilitar el sosiego y la estabilidad política imprescindibles para hacer frente

que tenemos en cartera y necesitamos que este

en lo importante y hacer bien las tareas que tenemos entre manos porque la estabilidad

por estar gobernando doce meses más es el clima político imprescindible para el crecimiento económico para la consolidación de los derechos conquistados en el pasado y para alumbrar lo que nos proponemos y lo que nos corresponde construir y a pesar

por si no se han enterado aun yo se lo reitero y es que los socialistas no vamos a desistir y como ni somos ni queremos ser como ustedes los socialistas no vamos a despreciar ni una sola de sus aportaciones la que euskal herria bildu quiera realizar ni una sola pero siempre que tengan

en el que nos movemos en este estado y en este país porque los socialistas creemos profundamente en un país donde ustedes también tengan cabida nosotros hemos respetado que ustedes gobiernen relevantes instituciones vascas a pesar de haber demostrado graves dificultades

y hemos sabido también encontrarnos en esa coyuntura política hemos llegado a acuerdos también con ustedes los socialistas nunca hemos acordado desde el veto ni desde la exclusión y por eso hemos estado siempre con ganas y en disposición con todos los grupos de esta cámara para hablar y tratar de acordar

los programas de las comarcas desfavorecidas para atender a los colectivos de trabajadores de empresas en dificultades para reformar e i te be para el decreto que regule el derecho a la vivienda que diseñamos de la mano para la ley también integral de la atención a víctimas de violencia de género

a pesar de ustedes mismos los socialistas tenazmente seguimos contando con ustedes porque pensamos que pueden aportar algo más que un sentimiento soberanista

les queda algún resquicio de la primera parte y se creen

los principios de igualdad el de la solidaridad y el de la justicia social y saben que nos necesitan que tanto afán por querer excluirnos

una izquierda que ha teñido de progresismo las políticas públicas durante los últimos cuarenta años y que es lo que seguiremos haciendo en las próximas décadas

los presupuestos del ciento cincuenta y cinco son los presupuestos que avalan y refuerzan en euskadi y ustedes que tanto defienden la independencia y su necesidad de reconocimiento en europa debieran pensarse también quizás en ese tablero de ajedrez

si llegará el caso para que la ley de estabilidad y las condiciones que se propone europa para la estabilidad presupuestaria

no somos nosotros los socialistas vascos quienes dejamos en duda nuestro compromiso ni con el estado ni con euskadi nosotros no somos los que prometemos el cargo

nosotros participamos de la elaboración de la constitución española nosotros participamos de la elaboración del estatuto como le digo no somos quienes prometemos los cargos por imperativo legal

a que realmente vamos a conseguir más recaudación que la que tenemos actualmente y no procede pero yo

de los dos grupos no es una posición absolutamente incomoda la que estoy manteniendo aquí durante

estoy comodísima yo siempre he pensado que los presupuestos siempre

se deben mejorar pero con la aportación de todos y las aportaciones sensatas y ustedes no la han hecho nos han pretendido borrar del mapa político

a ningún acuerdo ni con el partido nacionalista vasco ni con el partido socialista de euskadi por tanto yo estoy de acuerdo en apoyar

sí ahora mismo presidenta en apoyar unos presupuestos que supongan el devenir el futuro de euskadi y el crecimiento económico y el empleo para la ciudadanía vasca este a veces se suele decir no es mejor

pues en este caso no se trata ni de un mal acuerdo ni de que estamos en una situación para pleitos los socialistas vamos a hacer

no ha sido capaz de hacer a día de hoy y es construir un espacio en el que quepamos todos sin una sola medida ninguna ni una que discrimine a nadie por sus sentimiento
solo esa actitud nos va a permitir hacer un euskadi mejor nada más gracias por su tiempo eskerrik asko corcuera andreak

muchas gracias señora presidenta hoy once de diciembre hace treinta años que eta asesinó

en zaragoza a seis adultos y cinco niñas y hace veinte años que asesinó a nuestro compañero josé luis caso

pero hoy creo que vamos a celebrar también otra efeméride que es que el señor erkoreka no está en la cárcel tal y como al parecer pretendía

hoy votamos o no la devolución de los presupuestos del gobierno vasco y aquí todo el mundo habla de mayorías sociales pero la mayoría social es la que

que es la que han elegido los ciudadanos vascos en las últimas elecciones autonómicas las dos enmiendas

que es que están en contra de cumplir el principio de estabilidad del marco de consolidación fiscal o de incumplir los límites de déficit y de deuda

evidentemente somos partidarios de que el gobierno vasco cumpla las obligaciones que todos los vascos o la mayoría de los vascos no sé si social o no estamos de acuerdo en seguir en europa y en el euro y contestando ya simplemente a podemos con el tema de la educación le voy a dar la razón a la señora iriarte que es una vergüenza que casi el veinte por ciento de los vascos piensen

lo cual da una medida de la educación que tenemos que por cierto es la más cara de toda españa y es evidente que hace falta una reforma en esa educación y al hilo de lo que decían los representantes de podemos nosotros sí somos favorables a los conciertos en educación y en sanidad lo que me extraña es que ustedes tan favorables a la iniciativa social al tercer sector se opongan a esto o solo son favorables a la iniciativa social y al tercer sector cuando son suyos

y en cualquier caso hemos asistido a un debate que es falso falso desde el principio

realizando una reforma fiscal hace ocho meses se estaba evaluando la reforma fiscal anterior esa evaluación terminó antes del verano

planteando una reforma fiscal que a nosotros no nos gustaba y nosotros planteamos

no recuerdo que bildu planteara modificar esa reforma fiscal que venía lo que bildu planteaba era un cambio de gobierno no una alternativa de los presupuestos sí sí dijeron que salga el sol en el gobierno que no sé por qué ahora de repente llevamos aquí dos horas

esto lo leímos todos el psoe tenía que salir del gobierno y supongo que entrar ustedes en el gobierno supongo que están

nuestro mayor éxito en esta negociación no ha sido el tema fiscal nuestro mayor éxito es que ustedes no han entrado en el gobierno no han conseguido que el señor erkoreka esté en la cárcel

y nosotros como esto nos parece bueno para los vascos a parte de la estabilidad que tanto les molesta

modificar mucho más el presupuesto pero señor martínez no es nuestro presupuesto ni de lejos ni de lejos

otra cosa es que cada uno asume políticamente qué le interesa o qué quiere nosotros

lo vamos a conseguir con la reforma fiscal que hemos hecho lo vamos a conseguir con las enmiendas que se van a aprobar y además no nos parece bien y desde luego yo defenderé que el señor erkoreka siga en vitoria